presidenta lehendakari señorías escasas señorías

señorías los socialistas hemos traído esta proposición no de ley para que este parlamento salga indefensa de la

de los pensionistas y jubilados vascos y de los pensionistas y jubilados de españa

porque es un derecho adquirido y soportado por la ley la segunda porque son los pensionistas y los jubilados uno de los colectivos

y por lo tanto con más necesidad de que este parlamento de que esta institución salga en su defensa y la tercera porque han sido engañados

los socialistas queremos defender este posicionamiento institucional en favor

desde la firmeza y también desde la humildad desde la firmeza que nace de la convicción profunda de que estamos defendiendo en este momento una causa justa y noble y desde la humildad

que en el año dos mil diez nos equivocamos que tomamos una medida de congelación de las pensiones altas y que eso provocó una decepción en muchas personas

y de izquierdas y sobre todo en muchos pensionistas y jubilados

la mejor forma de salir de esa situación es defender

y con firmeza el derecho de los pensionistas a revalorizar sus pensiones he planteado que había tres razones

esta proposición no de ley a la cámara la primera sobre el derecho adquirido y soportado por la ley efectivamente la revalorización de las pensiones

sino que es fruto de un consenso recogido en el pacto de toledo y que debiera de ser sometido siempre en su revisión a un procedimiento similar por el cual se acordó esta forma de revalorizar las pensiones

porque el derecho de los pensionistas a la revalorización de sus pensiones se hace día a día semana a semana mes a mes y como bien establece la constitución

de retroactividad anulando aquellos derechos que en el tiempo se han ido consiguiendo por lo tanto hay un derecho que está adquirido y soportado por la ley hay un derecho que está adquirido y soportado en el consenso político y social de este país y a ambos planteamientos de carácter político y de carácter jurídico me parece que es una vulneración excesiva por parte del gobierno

imponerlo la segunda razón que he planteado es una razón de defender a los más vulnerables y efectivamente los pensionistas y jubilados uno de los colectivos más vulnerables del país el parlamento vasco por lo tanto debe de salir en su defensa porque están siendo sometidos a una injusticia no solo ya porque no se revalorizan las pensiones sino que también han tenido que sufrir una subida insoportable porque han tenido que sufrir la modificación la alteración

han sufrido el medicamentazo porque han sufrido el copago farmacéutico y porque han sufrido el copago sanitario el gobierno del señor rajoy el gobierno del partido popular está sometiendo a los pensionistas

en euskadi durante el gobierno anterior se han hecho muchas cosas y se han parado muchos de los recortes que venían también para aquí destinados los ciudadanos y ciudadanas vascas el gobierno anterior tuvo la voluntad y la determinación y contó en más de una ocasión con apoyos de esta cámara para defender desde el autogobierno los derechos y los intereses de la ciudadanía vasca y espero

podamos hacer algo similar y y espero también que a partir de hoy en lo sucesivo y con las siguientes políticas del nuevo gobierno también se use el autogobierno y también se use la decisión política para impedir que

sociales económicas aquellas políticas públicas aquellas políticas al servicio de la mayoría de esta ciudadanía vengan vulneradas cambiadas

que contará con el partido socialista para impedir que esas cosas se hagan la tercera razón que he planteado en la presentación de esta proposición no de ley es que el parlamento vasco quiere salir en defensa de los pensionistas y jubilados porque se ha querido abusar de ellos mediante el engaño el día diez de septiembre del año pasado

rajoy afirmaba lo siguiente si hay algo que no tocaré son las pensiones porque el pensionista es la persona más indefensa es el que lo tiene más difícil esto decía el señor rajoy días antes de esta afirmación la vicepresidenta del gobierno la señora

decía que se cumplirá la ley con las pensiones haciendo una afirmación rotunda a los comentarios que ya vaticinaban lo peor días después el secretario de estado de seguridad social afirmaba se van a subir las pensiones de acuerdo con el criterio vigente

que había dotación presupuestaria suficiente y que la polémica sobre pensiones era artificiosa para esto está sirviendo la mayoría

para engañar para vulnerar la ley y para gestionar los intereses del país en contra de la ciudadanía en contra

existe una enmienda transaccional que ha sido suscrita por nacionalistas y socialistas por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista

pero que también hay que señalar sobre ella que incorpora criterios de otros

sumado su apoyo a esta transaccional o alguna

plantear pero que sin embargo están en la misma línea en el mismo eje y de decisión a tomar por este parlamento en defensa de los pensionistas y jubilados y por eso una de las cosas que

planteo es que lo hagamos como nos parezca más razonable la decisión final pero creo que podemos sumar

en el aspecto más sustantivo de lo que estamos tratando que es defender que los pensionistas y jubilados tienen derecho a su revalorización de pensiones que

en su defensa y por lo tanto si hay que votar por puntos o hay que hacerlo

está abierta la oportunidad de suscribir esta enmienda transaccional hagámoslo así porque

esperan de nosotros los ciudadanos y ciudadanas que están siguiendo en estos momentos este debate o que están

resolución política una determinación por lo tanto espero que pueda a la suma a la mayoría

por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista se puedan sumar más apoyos de esta cámara muchas gracias eskerrik asko prieto jauna jarraian

y garantizar unas pensiones dignas pero mientras afirma lo anterior sí hay dinero y mucho para ponerlo al servicio de los bancos solo voy a dar un dato

la no actualización de las pensiones llevará a ahorrar tres mil millónes de euros mientras que la cantidad que se les da a los bancos

también se puede hacer otra política en materia de pensiones es posible lo que hace falta

en este momento es voluntad de tomar decisiones políticas en este sentido adostutako testuan alderdi sozialista

ordua da hori ekintzekin ere martxan ipintzeko mientras no tengamos la competencia total para gestionar las pensiones proponemos medidas compensatorias medidas para que los recortes del gobierno de españa no afecten al poder adquisitivo de este colectivo proponemos que en el proyecto de presupuestos del dos mil trece se recoja una partida presupuestaria concreta para paliar la pérdida de este poder adquisitivo porque tener una pensión digna

un nivel adecuado de bienestar derecho que deberían de garantizar las administraciones públicas bide horretan pertsona nagusien pentsionisten

gracias presidenta efectivamente nosotros estábamos básicamente de acuerdo con la letra y con el espíritu de la iniciativa planteada por el señor

pero sí que es cierto que quisimos mejorarla y creo que en parte la hemos mejorado vista la enmienda transaccional a la que han llegado con el grupo nacionalistas vascos porque efectivamente pensábamos que había margen para la mejora y por eso presentamos nosotros una enmienda de totalidad de cuatro puntos el primero de los puntos lo que

y más precisa de lo que es de aquello de lo que estamos hablando por eso proponíamos que el parlamento vasco rechace la decisión del gobierno de españa

de dos mil doce así como la no revalorización de las pensiones en el año dos mil trece de acuerdo con el ipc previsto para el citado año

es más correcta y técnicamente creo que está mejor

punto lo que proponíamos es que el parlamento denuncie el especial daño que se hace a los pensionistas por incidir en un colectivo especialmente vulnerable y añadíamos un colectivo que ya ha sufrido anteriores recortes en sus prestaciones y efectivamente esto no se ha

el grupo socialista es decir coincidimos con el grupo socialista en señalar la especial vulnerabilidad de este colectivo pero queríamos recordar además que este colectivo ya ha sufrido anteriores recortes en sus prestaciones

también por el gobierno socialista por tanto rechazo a una medida injusta y regresiva del gobierno central

que afecta a miles de pensionistas vascos y españoles rechazo una medida contra las personas que menos culpa tienen de la crisis contra las personas

con sus obligaciones y contra las personas como decía que ya llevan tiempo sufriendo recortes en sus derechos el tercer punto de nuestra enmienda

concretamente apoyar el recurso de inconstitucionalidad ya interpuesto por varios grupos del congreso de los diputados y efectivamente esto se ha incorporado también a la enmienda transaccional del grupo nacionalistas vascos y grupo socialistas y finalmente

incorporar con nuestra enmienda de totalidad un asunto que me parece

al pacto de toledo y por eso proponíamos que el parlamento vasco considere

que el pacto de toledo el consenso social y la voluntad de mantenimiento de un sistema de protección suficiente

en la consolidación del sistema público de pensiones por lo que se insta al gobierno de españa a no volver a realizar actuaciones unilaterales en esta materia esto también ha sido incorporado a la enmienda transaccional de hecho después ha sido incluso mejorado cuando se habla de protección social suficiente universal

y ya digo que aunque básicamente estábamos de acuerdo queríamos mejorar en lo que pudiéramos creo que en parte lo hemos conseguido dando especial relevancia

inspira su funcionamiento control y destino en el llamado pacto de toledo

en el que todas las fuerzas políticas y agentes sociales se comprometen a consensuar cualquier movimiento o cambio en la seguridad social desde entonces la seguridad social española ha adquirido una solidez que en nuestra opinión es claramente envidiable es la administración seguramente más estable eficaz

en españa el objetivo del pacto de toledo era evitar que la lucha partidista los intereses de siglas se situasen por encima de los intereses de la seguridad social

el mecanismo llevado a cabo durante todos estos años ha sido el mismo en el seno de una comisión parlamentaria se elaboraba un dictamen que tenía en cuenta el presente y el futuro de la seguridad social adelantando una serie de recomendaciones para mejorar y potenciar el sistema

eran aprobados en el pleno del congreso de los diputados posteriormente el gobierno preparaba un paquete de medidas normativas para llevar las recomendaciones a derecho positivo eran consensuadas con los agentes sociales y finalmente las medidas normativas esta es una manera de consensuar buscar la complicidad de todos los afectados y ser respetuosos con los ámbitos de competencias institucionales esto es lo que debería protegerse y lo que nosotros también queríamos poner en valor a través de nuestra enmienda de totalidad lo cierto es que los peores momentos que ha vivido la seguridad social han sido precisamente cuando el gobierno de turno sea socialista o popular

del consenso y ha regulado materias al margen de las recomendaciones y acuerdos del pacto de toledo fundamentalmente dos han sido las materias sobre las que los gobiernos españoles ha incidido sobre la seguridad social de manera partidista y al margen del consenso

sobre la actualización de las pensiones públicas y actuando para impulsar recortes sobre la revalorización de las pensiones en este momento el actual gobierno de españa ha hecho

después de engañar a la ciudadanía por un lado ha suspendido la actualización de las pensiones y por otro lado ha resuelto revalorizar las pensiones en dos mil trece lejos del ipc previsto para este año por lo tanto como digo una decisión regresiva e injusta que nosotros queremos rechazar por lo tanto nosotros estamos de acuerdo con los cuatro primeros puntos de la enmienda transaccional si hay posibilidad nosotros votaríamos a favor de esos cuatro puntos lo que no compartimos

porque además pensamos que no es asunto para el debate de hoy pensamos que efectivamente

al estatuto de autonomía y la transferencia de la gestión del régimen económico porque al fin y al cabo transferir una gestión exclusivamente no mejora absolutamente nada de la seguridad social estaríamos hablando en todo caso de la gestión de la seguridad social y es obvio que la simple gestión no mejoraría para nada la calidad de vida de los pensionistas vascos por lo tanto la gestión del régimen económico de la seguridad social nada tiene que ver

por las cuales votaríamos a favor de los cuatro primeros puntos

en la que propone que instemos al gobierno de españa ha seguir adoptando medidas eficaces lo cierto es que tenemos que decirles

impulsando este tipo de medidas que han venido impulsando durante los últimos meses que son cualquier cosa menos eficaces y que por favor presenten cuanto antes

aunque solo sea una medida eficaz para luchar contra la crisis porque lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un gobierno central que no ha hecho más que impulsar

sailburua arratsalde on legebiltzarkide guztioi quienes no subieron las pensiones cuando gobernaban mejor dicho las congelaron

mejor dicho la desfachatez de presentar una iniciativa rechazando la decisión del gobierno de españa de subir las pensiones claro

y contaron con el estimable apoyo de algún otro grupo como el grupo nacionalista vasco de lo que sin duda

que por aquel entonces fueron protagonistas de mucho de los acuerdos con zapatero entre ellos el de la congelación de las pensiones

o la rebaja del sueldo a los funcionarios entre otras cosas porque ustedes apoyaron los presupuestos del señor zapatero alderdi popularrak

egon hay que volver a recordar que en otro escenario más favorable del anterior gobierno el gobierno del partido socialista decidió congelar las pensiones

eta bi mila hamairuan ehuneko bia el consejo de ministros de treinta de noviembre

aprueba el real decreto ley de medidas de consolidación y garantía de la seguridad social por el que se decide la revalorización de las pensiones de los españoles para dos mil doce y dos mil trece en un uno por ciento para todas y un dos por ciento en dos mil trece para los que no superen los mil

aurrikusita baino debido a los momentos

conforme a la inflación actualizarlas conforme a la desviación del ipc

y todos ustedes señorías lo saben pero no ha sido posible teniendo en cuenta la evolución del número de cotizantes a la seguridad social los gastos ingresos y cual era el ipc de noviembre

han sido y son una prioridad para este gobierno por ello es la única partida

que por cierto ustedes los socialistas nos dejaron

el fondo de reserva de las pensiones fondo creado en mil novecientos noventa y siete también por el gobierno del partido popular para afrontar

flexibiliza el uso del fondo para atender el déficit que pueda existir este fondo como salvaguarda del sistema de pensiones se podrá destinar al pago de las pensiones de carácter contributivo

en situaciones estructurales de déficit alderdi popularrak

el pp mantiene su compromiso con los pensionistas y lo seguirá manteniendo en el futuro las pensiones en españa están garantizadas gracias al compromiso y a las decisiones que está adoptando el gobierno del partido popular

no como hicieron los socialistas con este pacto señor prieto se van a seguir pagando las pensiones

revalorizando y se van a cumplir los objetivos de déficit no traten de confundir de despistar a los ciudadanos y generar el alarmismo que tanto les gusta sembrar

afortunadamente los ciudadanos tienen memoria y ya les conocen lo suficiente aquí el único gobierno que congeló las pensiones no aplicó la desviación del ipc

ni un euro ha sido el gobierno del psoe de zapatero

estas no eran injusticias señor prieto las pensiones se han tocado para subirlas ustedes

entonces cuando congelaron las pensiones no les pareció tan intolerable y una agresión sin precedentes hacia las personas mayores por utilizar alguno de los términos de la justificación

ciento treinta millónes de euros de excedentes del sistema en los años dos mil ocho dos mil nueve

estaba en superávit para atender otros compromisos de gasto esto supone cinco veces más

a parte de dar las explicaciones que a día de hoy no han dado todavía

y sobre dónde fueron los excedentes del sistema durante los años dos mil ocho y dos mil nueve también convendría que explicaran por qué en dos mil once dejaron la seguridad social en números rojos con un agujero de siete mil setecientos millónes de euros

ya que nos dejaron en el año mil novecientos noventa y seis una seguridad social en quiebra en números rojos quinientos mil millónes de las antiguas pesetas por tanto

sino también en buena parte de que no podríamos llegar a revalorizar las pensiones de acuerdo a la subida del ipc ya que los treinta mil millónes de euros de déficit que se dice pronto señor prieto que dejaron nos hubieran dado para muchas revalorizaciones

ahora resulta que el partido socialista que en su momento congeló las pensiones plantea un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del partido popular de subir las pensiones

ninguna credibilidad es de un cinismo que roza el esperpento por cierto a la posible inconstitucionalidad del real decreto ley y respecto a las consideraciones que usted ha hecho del derecho adquirido me gustaría comentar algunas cuestiones el sistema de seguridad social será el que corresponda según las leyes de cada momento en función de las posibilidades económicas y financieras del sistema la reiterada doctrina del constitucional sostiene que en materia de seguridad social

no existen derechos consolidados toda vez que la cuantía de las prestaciones está condicionada por las posibilidades del sistema en este sentido el tribunal constitucional

al legislador la determinación de la cobertura a otorgar por el sistema público de la seguridad social de manera que el legislador teniendo en cuenta las circunstancias existentes puede determinar cómo se va a atender las distintas situaciones de necesidad sin duda teniendo en cuenta el contexto general

la previsión del artículo cuarenta y ocho de la ley general de seguridad social que ustedes invocan estaría condicionada primero a las posibilidades económicas del sistema

ante un sistema de reparto y segundo a las previsiones que se incorporen en la correspondiente ley de presupuestos en definitiva no estando

absolutamente falsa desde el punto de vista cuantitativo

o incluso puede no llevar a efecto las previsiones contenidas en normas anteriores si tal cumplimiento

con el gobierno del partido popular no se despilfarra como han hecho otros gobiernos

son no gastar más de lo que se ingresa cumplir con los objetivos de déficit luchar contra el fraude y subir las pensiones entre otras cuestiones

suponen un verdadero ejercicio de responsabilidad que permitirá cumplir con el objetivo del déficit público indispensable para que españa pueda conseguir financiarse emprender la salida de la crisis y volver a la senda de crecimiento económico generador de empleo auténtica garantía de la protección

de los españoles azken finean ongizate estatuaren

hay una enmienda de transacción que el partido popular votará en contra suma recoge los puntos

la enmienda del partido socialista y sí que sorpresivamente vemos que hay un punto en el que se insta al gobierno de españa a que se proceda la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social

viene firmada por el partido socialista y el partido nacionalista vasco pero teniendo en cuenta que los acuerdos de congelación de las pensiones

reducción del sueldo de los funcionarios y del apoyo de los presupuestos que permitieron

se vulnera por ejemplo el contenido esencial del artículo cuarenta y uno de la constitución que establece el sistema de seguridad social y proclama las características del servicio

con las características de carácter público del mismo suficiencia de las prestaciones y de universalidad no se cumple el mencionado

configura la ley general de la seguridad social y establece que la revalorización se tiene que producir de forma automática y utilizando como referencia el ipc

noiz egin zen eta ondoren zer gertatu zen y no es la primera vez efectivamente que los

suspendió la revalorización de pensiones para dos mil once excepto las no contributivas y las mínimas así hemos visto como entre unos y otros

el pacto de toledo por eso consideramos oportuno recordar que el pacto de toledo ha sido pieza importante en la consolidación del sistema público de pensiones instar al gobierno a este y al que vaya haber en un futuro a no volver a realizar unilaterales en esta materia indudablemente hay que reducir el déficit público y cumplir con los objetivos fijados pero no todo vale para ello

se refiere a la capacidad de sufragar de costear las necesidades ordinarias de la vida toledoko itunaren jarraipena egiteko batzordean

de inconstitucionalidad al real decreto ley veintiocho barra dos mil doce de treinta de noviembre de medidas de consolidación

de la seguridad social por el que se suspende la revalorización de las pensiones eusko alderdi jeltzaleak uste du errege dekretu legeak ez duela pasatuko

eta horrek benetan pozten gaitu nos alegramos de que este punto haya sido incorporado a la enmienda transaccional porque la materia de la seguridad social

al gobierno vasco euskadi tiene derecho a ejercer la competencia estatutaria de seguridad social maneiro jauna

ha hecho referencia a que la gestión del régimen económico de la seguridad social en nada mejoraría

de vida de las vascas y de los vascos desde el partido nacionalista vasco consideramos y tenemos que destacar que cada vez que euskadi ha recibido una transferencia se ha mejorado

tanto en eficacia como en algo tan importante como la cercanía y la agilidad y en estos momentos señor maneiro más que nunca

por eso hoy nos alegramos de que también otros grupos políticos reclamen su transferencia porque la transferencia de la seguridad social es una cuestión esencial para la profundización del autogobierno de euskadi para la consolidación

y en definitiva para atender mejor socialmente a las vascas y a los vascos uste dugu gehienok sinatzeko moduko erdibideko zuzenketa dela

bitan habéis reconocido errores lo cual os honra pero es un treinta y tres por ciento de errores esperamos que sea solo algo

gracias presidenta señora arrondo hoy coincidimos en lo fundamental que es la revaloración de las pensiones que es el objeto

y luego efectivamente hay un par de divergencias una relacionada

efectivamente no estamos aquí en un debate de competencias no estamos en un debate o por lo menos no es el espíritu de la

aunque puede formar parte del debate porque sus señorías así lo consideran y así se está haciendo ahora bien sobre esas diferencias permítame que le diga dos cosas la primera yo creo que una de las cosas

tiempo o un primer momento como lo quiera definir yo creo que las barbaridades sociales que está haciendo el partido popular no tenemos por qué pagarlas a escote o pagarlas dos veces es decir el gobierno de españa decide que no se revalorizan las pensiones que no se

actualizan en relación con el ipc previsto y la idea inmediata que se nos puede ocurrir a nosotros es además de pagar las cotizaciones a la seguridad social y pagar nuestros impuestos vayamos a poner las cantidades necesarias para complementar ese dinero que falta

es un debate al que no nos negamos tampoco creo que el partido nacionalista vasco

el señor urkullu en campaña electoral dijo que se comprometía a poner cincuenta millónes de euros

para poder compensar o revalorizar las pensiones mínimas en la cuantía

a hacer una iniciativa de carácter social económico en el marco de los presupuestos o en el marco de medidas

estamos iniciando el año es el momento de exigir al gobierno de españa que cumpla él con su obligación con las obligaciones que están en las leyes

que cumpla la constitución y que revalorice las pensiones que cumpla sus promesas y que

por los engaños a los que ha sometido a los pensionistas a lo largo de afirmaciones claras como las del

porque quiso y efectivamente engañó y luego ha habido toda una cadena de engaños en relación con quién gestiona las pensiones pues ya sabe que en eso no tenemos acuerdo y menos con la que está cayendo

por citar el último año del que hay referencia completa en datos

sistema de pensiones y hemos recibido

un déficit que viene acumulándose en distintas cuantías desde el año dos mil cinco y que además

muchos pensionistas cuando llegan a la edad de

se van a otros lugares a vivir y por lo tanto es en el lugar donde residen donde deben ganar la pensión si además también la devengaran todos

probablemente el déficit sería todavía muchísimo mayor por lo tanto no es un asunto menor

señor lehendakari asiente con la cabeza porque efectivamente si cae la recaudación si hay

y si además hay que soportar otro tipo de situaciones no previstas las cosas se complican bien

rápidamente tendría alguna cosa más que decir pero discutiremos en otro momento señor maneiro por mi parte de acuerdo porque se vote por puntos y señora garrido

cicerón dijo que todos los hombres podemos caer en un error pero que

nosotros hemos hecho de entrada una invocación al error cometido en el año dos mil diez y hemos dicho que con toda humildad veníamos a defender

pero también quiero recordarle que hay una ley de leyes que dice algo así como

cuando los hechos estén en su contra invoque la ley y cuando la ley y los hechos estén en su contra

y es un poco lo que ha venido a hacer aquí porque mire voy a terminar en treinta segundos con la autorización de la presidenta a finales del año dos mil diez en esta cámara

el señor damborenea trajo una moción una proposición no de ley que decía respetar el derecho de los pensionistas a la revalorización de las pensiones establecido por ley

manteniendo así su poder adquisitivo es decir en el año dos mil diez era un derecho y el señor damborenea trajo aquí este planteamiento sabe cómo acabó aquel debate

estaba discutiendo con josean pastor

y entonces la última frase del señor damborenea no la recordará se ha marchado porque la verdad es que es bastante fuerte

se dirigía al señor pastor y le dijo qué quiere que le diga nuestra alternativa y afirmó no robar

no compartimos cómo se hacen los cálculos del déficit de lo que se cotiza y de lo que se recoge que también posiblemente será y habrá ocasión de hablar

partido nacionalista vasco y luego en usted señor prieto porque desde luego ha dicho unas perlas hoy que se van a quedar en la hemeroteca para que las recordemos aparte de señor maneiro le haya recordado algunas cosas al señor prieto que han estado muy bien

uno no gobierna en ningún sitio pero es que los ciudadanos nos han votado y por mayoría absoluta para que tomemos decisiones y para que arreglemos el desastre que nos han dejado otros

pero bueno espero que esto sea el principio de un buen comienzo

hoy está presente aquí el señor urkullu que en muchas ocasiones

presente me va a permitir ya que como lehendakari con todo el respeto obviamente se lo diga no sé si usted viendo la debilidad de zapatero y porque quería también aquí

la transferencia de las políticas activas de empleo entonces ni el señor lópez

defendían el autogobierno porque esa transferencia se demoró un año simplemente porque el señor urkullu se lo plantea así como exigencia al señor zapatero entre otras cuestiones señora gorospe cuando congelaron las pensiones

medidas y fueron de la mano con el señor zapatero y señor prieto mire lo que hicieron es que además no se lo he recordado yo aquí en esta tribuna sola se lo han recordado todos los representantes que han salido aquí a hablar

que por situarse están haciendo cualquier cosa incluso poner lo de la transferencia a la comunidad autónoma del país vasco de la gestión del régimen económico de la seguridad social

que ustedes nos dejaron ese déficit que era mayor del que ustedes nos dijeron pagar la deuda

pero es que aparte también subía la de la deuda que es para pagar la deuda esa que ustedes nos dejaron los dieciséis mil millónes de euros

todo lo que tocan lo dejan como lo dejan también nos dejaron la seguridad social quebrada en el año mil novecientos noventa y seis

como lo han dejado y los ciudadanos que no son tontos saben lo que hicieron

en la oposición y desde luego es absolutamente incongruente

y roza el esperpento congelar las pensiones y presentar una iniciativa

y luego presentar una iniciativa para rechazar la decisión del partido popular de subir las pensiones cuando ustedes las congelaron mire

es que nosotros ponemos orden en las cuentas en las cuentas de la seguridad social separando las fuentes de financiación el fondo de reserva se va a usar con absoluta transparencia y se ha dado garantía al sistema ustedes en cambio congelaron las pensiones

también dejaron déficit en las cuentas esos dos puntos más de los que nos dijeron y abrieron

de atrás y eso lo saben los ciudadanos le voy a recordar

porque la memoria es frágil pero la hemeroteca y lo que cada uno décimos

decía el señor zapatero que defendía la congelación de las pensiones promovida para estabilizar el mercado de la deuda que se ve actuado con coherencia

en el parlamento vasco en este caso para rechazar la decisión del gobierno de españa del partido popular que es el que ha subido las pensiones cuando ustedes las congelaron decía que se había actuado con coherencia decía por aquel entonces el señor zapatero para la credibilidad de la política española

que no los había obligado nadie y que tomaba la decisión para recuperar el crecimiento

y que se hacía por el bien de españa tal cual señor

mire muchas de las decisiones que estamos tomando y que se está tomando con absoluta responsabilidad y valentía el gobierno del partido popular y como le he indicado es para

ustedes son decisiones delicadas pero son decisiones absolutamente imprescindibles indispensables para como le decía arreglar el desastre que ustedes nos dejaron y para

la estamos recuperando por lo menos a los ojos de europa y para volver a la senda de crecimiento y desde luego si no hubiéramos tomado muchas de las medidas que estamos tomando los españoles estaríamos en una situación peor y parece que el partido socialista solo tiene ideas cuando otros les deja las cajas llenas eso sí solo tienen ideas para despilfarrar y para derrochar

y nos han votado para tomar decisiones y hacer cosas que desde luego para arreglar el desastre que ustedes nos

resultado de la votación setenta y cuatro votos emitidos sesenta y cuatro votos a favor diez votos

a favor diez votos en contra ondorioz onartuta geratzen da hirugarren puntura bozkatu daiteke

resultado de la votación setenta y cuatro votos emitidos cuarenta y dos votos a favor

zurea da hitza muchas gracias señora presidenta como todos ustedes saben la caída de ingresos públicos

en los últimos años y la conclusión en todas ellas o en casi todas ellas porque siempre hay excepciones es que se ha incrementado la deuda de todas las administraciones públicas hasta unos números que en algunos casos la hacen inviable el problema surge cuando hay que pagar esa deuda

del gasto público de cada una de las administraciones y por ello llega un momento en el que hay que poner orden en las cuentas y ese déficit llevarlo a niveles sostenibles eso sin necesidad de que nadie nos diga nada ni desde bruselas ni desde madrid eso

lo sabe no hace falta que nadie vaya a decirle que si tiene que pedir créditos para comprar comida va a terminar

y en una comunidad autónoma o en un país como ustedes quieran llamarlo como es este ocurren exactamente lo mismo que en una familia o que

si además nosotros hemos querido y desde luego algunos seguimos queriendo tener unos socios y entre todos ellos hacer una moneda única que se llama

porque beneficia a las empresas beneficia a la economía y favorece el empleo pues es evidente que además tenemos que cumplir los compromisos que tenemos con nuestros socios

el gobierno vasco ha cumplido los criterios de déficit que tenía fijados para el año dos mil doce ya que desde el mes de octubre pasado este parlamento

ni del anterior gobierno ni del nuevo gobierno pero también es evidente que en algún momento llegará esa información económica sí sabemos por contra que en el mes de marzo pasado el gobierno vasco

el llamado plan económico financiero de reequilibrio dos mil doce dos mil catorce de la comunidad autónoma vasca

y cuando alguno hoy lo repasa ese plan de equilibrio

que preveía preveía incluso durante la ejecución del presupuesto algo tan peregrino pero bueno lo preveía

de ingresos los datos que nosotros hemos visto ya repito a octubre era que nos habíamos gastado treinta y seis millónes de euros más

sino que nos habíamos gastado treinta y seis más a octubre con lo cual pequeño agujerito de cien millónes de euros entre lo que íbamos a ahorrar y lo que hemos gastado de más solo en esa partida por no hablar del gasto de farmacia

o por no hablar de la previsión de ingresos fiscales que se iba a incrementar habida cuenta de la subida de impuestos que se había producido en diciembre del año anterior bueno todo eso ya sabemos que no ha sido así por lo tanto

pero permítanme que lo dude porque si ya solo con esos datos

mal iba el plan que se presentó si las previsiones que tenía tampoco se cumplen y voy a recordar que para este año dos mil trece la previsión era

y resulta que el nuevo gobierno nos dice que no solo no vamos a crecer el uno coma uno por ciento sino que vamos a bajar

el uno coma uno una cifra mágica ya sea al alza o a la baja pero en el que coinciden los dos gobiernos en cualquier caso cada punto de pib nos supone una pérdida de unos ochocientos millónes de euros con lo cual parece que el nuevo gobierno va a tener otro problema añadido

cuanto antes y nosotros por eso porque es importante pero es importante para nosotros para los vascos tener unas cuentas saneadas lo que le instábamos al gobierno vasco

a que cuanto antes presente el presupuesto pero sobre todo que lo presente evidentemente cumpliendo los objetivos de déficit que tenemos marcados que tenemos marcados porque además nosotros nos los hemos dado cuando hemos oído argumentos últimamente

que no está muy dispuesta o que dice no estar muy dispuestos a cumplir el objetivo de déficit

cuando todos saben que no tendrían efectos hasta el año dos mil catorce en el mejor de los casos si lo tuvieran por lo tanto no soluciona nada salvo que estemos hablando de subir otra vez el iva entonces sí me gustaría que si alguien va a plantearnos lo de subir impuestos nos diga

y que lo planteen donde se puede plantear que es en el congreso de los diputados y evidentemente a lo mejor el señor montoro tal y como está últimamente igual hasta hace caso a aquellos que están planteando que hay que subir los impuestos para cuadrar las cuentas

porque es que la deuda es injusta y estos otros que dicen que no hay que pagar la deuda porque es injusta

es decir estos son unos fenómenos que pululan también por este país

pero además vamos a pedirles más dinero prestado para seguir gastando luego cuando llegan a gobernar a alguna institución resulta que no lo hacen

no se aplican la receta teniendo en cuenta que además si yo no recuerdo mal alguna de esas instituciones es la más endeudada de todas las administraciones

con la enmienda de transacción a la que hemos llegado porque el gobierno si parece dispuesto a cumplir con los criterios

hay una cosa que no entendemos sobre todo del grupo socialista

hasta hace dos meses que uno de los

eran para cumplir los objetivos de déficit y se nos presente una enmienda de un tenor que es que el partido socialista acaba de aterrizar en esta cámara no ha gobernado nunca

se empiezan a parecer cada vez más a los señores de bildu que tampoco han estado nunca por aquí ninguno de ellos

que nos dicen el parlamento vasco insta al gobierno vasco a defender y reclamar ante el gobierno de españa y las instituciones una política objetiva de déficit consensuados en vez de impuestos

es que esto es parte de su herencia o no recuerdan el año pasado a mariano rajoy cuando todo el mundo le decía traiga ya los presupuestos y decía no puedo porque es imposible cumplir porque ustedes se han pasado con el objetivo hay que renegociar primero el objetivo de déficit

los que nos vinculan a todos cómo se puede venir ahora diciendo que hay que revisar lo que nos han impuesto lo que nos han impuesto ustedes en la negociación que ustedes hicieron en bruselas

y además que coopera la inversión pública en vez de anularla ni voy a comentar y que no se desmantelen los servicios públicos

pero si dentro de eso que ustedes pactaron en bruselas que no se lo impusieron bruselas lo que dice es cuál es el objetivo de déficit no cómo deben hacer ahora si ustedes lo incumplen al final dirán como lo tienen que hacer sobre todo

pero usted me va a empezar a cumplir algo de lo que no ha cumplido hasta ahora porque estamos así como estamos por cómo han cumplido ustedes las cosas nos decía que

después de negociar estos objetivos no solo congelaron las pensiones bajaron sueldos de funcionarios

dónde estará el dinero que falta en la caja de la seguridad social dónde está y estamos hablando de miles de millónes de euros

porque si ese dinero llega a estar en la caja de la seguridad social hoy se podrían haber revalorizado más las pensiones de los pensionistas pero no está

y no está porque el partido socialista en el gobierno de españa en qué se lo ha gastado pero no ha ingresado ese dinero en la caja de la seguridad social y dónde están esos miles de millónes de euros alguien tendrá que explicarlo en este país

segundo punto que hay que denunciar los abusos de la derecha de alemania con los grupos financieros

que los alemanes sí claro pero por las decisiones que tomaron ustedes estando en el gobierno o no se acuerdan ustedes que teníamos un sistema financiero que estaba en la champions league

la banca española era fantástica y las cajas de ahorro más y ahora qué pasa que según salen del gobierno resulta que todo eso no solo en la caja de la seguridad social falta dinero

el cincuenta por ciento está quebrado y hay que pedir dinero a bruselas y que te lo porque claro cuando los demás países europeos lo hacían nosotros

y ahora nos dicen ustedes que por qué pagamos cinco y seis veces más la deuda que los alemanes pues porque nos han endeudado tanto que al final cuanto más dinero se pide pues más interés se paga eso lo sabe todo el mundo

nos dice que se exija al gobierno de españa la negociación y el consenso para fijar los objetivos de déficit del país

y en el gobierno de españa los han fijado ustedes son ustedes el partido socialista desde el gobierno vasco y desde el gobierno de españa los que han dicho los objetivos de déficit para el país vasco son estos

cómo vienen ahora planteando estas enmiendas y luego la última esta tiene tela

porque le instamos al gobierno vasco a proponer a todas las instituciones del país una iniciativa europea que resuelva que nuestro coste de deuda sea igual al que soporta alemania y reino unido

bien bien ocho años de gobierno del señor rodríguez zapatero plegado

cumpliendo religiosamente lo que por lo visto le decía la derecha alemana porque

fue que europa no funcionaba como funciona ahora

en europa alemania era muy importante francia era muy importante pero españa pintaba algo entre otras cosas porque tenía algunos socios fiables

al gobierno de españa su prioridad internacional fue un tal morales un tal chávez y luego a la hora de ir a bruselas lo que diga la señora merkel pues claro que nos vengan ahora diciendo

el mismo tipo de interés por la deuda nos parece muy bien pero podían haber hecho ustedes algo y cuando digo que podían haber hecho algo es porque el que está intentando hacerlo ahora es el señor mariano rajoy en fin sin gran ayuda de momento

ni europeos pero es el único que está intentando que el banco europeo tenga competencias reales como las tiene la reserva federal de estados unidos o como las tenía en su momento el propio banco de españa por eso le digo

la enmienda que nos han planteado ustedes habiendo salido del gobierno hace tres meses

incomprensible y demagógica y parece que acaban de aterrizar y en fin nos conocemos todos desde hace varios años porque nos sentamos en estos escaños desde hace varios años

que espero de este debate es que si el gobierno vasco de verdad está dispuesto a cumplir los objetivos de déficit

señora presidenta señorías señor damborenea usted

explicaciones y me ha sugerido dos cosas primero que no se ha enterado que en españa gobierna el partido popular desde hace quince meses y por lo tanto

igual que otros miembros de su grupo todas las intervenciones con el pasado parece que no tienen nada que contarnos ni ninguna responsabilidad adquirida

a la sociedad y en segundo lugar usted toma la iniciativa de presentar una proposición no de ley la trae aquí habla medio minuto de la proposición no de ley porque

muy poco fundamento lo que está haciendo y se dedica

una enmienda y con unos cuantos puntos para que usted se recree

porque desde luego su iniciativa política no tiene ningún recorrido político y usted lo ha demostrado aquí no sabiendo qué decir y qué argumentar

en segundo lugar que es de mal gusto y en tercer lugar que es una iniciativa sin alma y además no se ajusta a la realidad de los hechos

el déficit es un déficit que se ha impuesto que no se ha negociado que no se ha consensuado es un déficit que se ha hecho exactamente igual para todo el mundo que no ha tenido en ninguna de las comunidades autónomas en cuenta cuál erá la situación real de su economía en ese aspecto lo que más me extraña es que finalmente el partido nacionalista vasco haya llegado a un acuerdo con ustedes

me imagino que los márgenes con los que quisiera gobernar cualquier gobierno y en este caso el nuevo gobierno debieran de ser unos márgenes mayores como hacen otros

esta política de déficit europea y esta política de déficit española pero mire es innecesaria porque la política de la derecha europea del déficit ya es un error

es algo que ya cualquier analista con un poco de rigor cualquier servicio de análisis incluso las instituciones europeas se lo están empezando a plantear

algunos miembros ya de la comisión europea y que por lo visto ustedes como no leen los periódicos como no se informan por lo que acaba de decir aquí no tienen en cuenta

no un clamor popular es un clamor institucional que es una salvajada la política de déficit que se está haciendo en europa desde el punto de vista social y por lo tanto es totalmente innecesario que sobre algo que hay que rectificar porque constituye ya un fracaso de política económica y de política social usted venga

a regodearse con esta iniciativa con esta

es de mal gusto porque ustedes

el déficit donde les da la gana y si quiere repasamos comunidad autónoma por comunidad autónoma y miramos que están haciendo en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan

lo van a incumplir en más del doble en varias comunidades autónomas de este país que gobiernan ustedes y que llevan muchos años gobernando y que es ahí

donde más déficit ha habido y donde más déficit se ha incorporado al déficit general de este país

es de muy mal gusto no saber hacer las cosas que uno quiere exigir a los demás saltárselas cargárselas y además venir aquí a dar

y es sin alma es una iniciativa sin alma porque detrás de este objetivo frío de esta cifra fría que usted plantea y que la derecha está permanentemente planteando hay tantos dramas

para tantos años que por lo menos si tuvieran un poquito de sensibilidad social se lo replantearían y no hablarían

y con esa insensibilidad del déficit de la política del déficit del desastre de la política del déficit

no porque no haya dinero sino porque invocando una crisis económica una crisis que nace de la especulación y del robo del sector financiero y del sector inmobiliario invocando esa crisis económica

institucional en la que se está repartiendo la riqueza de tal manera

hay algunos que tienen muchísimo más dinero y una inmensa mayoría que tiene menos medios para vivir menos medios para el empleo y menos medios para proteger

ustedes no dicen nada salvo que solamente hay que cumplir con ese déficit impuesto y con ese déficit y esos planteamientos de deuda y de coste de deuda impuestos por los especuladores impuestos por aquellos que les da exactamente igual como les da exactamente igual a ustedes el futuro de millónes y millónes de personas por lo tanto señor damborenea para qué quiere usted austeridad para qué quiere usted ajuste para qué quiere usted el recorte de gasto

para qué para que siga habiendo más parados para que siga habiendo más desahucios para que siga habiendo más eres para que siga habiendo más recortes

para eso quiere usted la política del déficit si por lo menos hubiera algún resultado noble si hubiera algún resultado social si hubiera la búsqueda de algo que sirve para intentar paliar las estrecheces las dificultades y la situación

no ha habido ni una sola política de estos dos últimos años que haya podido ayudar desde esas directrices de política europea a salir de la crisis económica ustedes para llegar a este incumplimiento porque lo están incumpliendo del déficit en muchos sitios recortaron la sanidad al diecisiete por ciento y después le metieron otro bocado

recortaron la educación en el veintiuno por ciento y después le metieron otro bocado

como acabamos de hablar en la pnl anterior no han revalorizado las pensiones y sigue la misma situación y por cierto

y que la señora garrido no ha tenido el valor de contestarlo aquí cuando usted dijo en esta cámara que la política de no revalorizar las pensiones era robar a los pensionistas

rectifique porque sino usted está ayudando a robar a los pensionistas

de esta cámara pero mire le voy a decir más cosas porque veo que el tiempo y las ideas muchas mire el instituto de macroeconomía y estudios coyunturales de alemania

y salarial mire un reciente informe del fondo monetario internacional dice que los ajustes se han pasado de frenada porque

que se gasta públicamente es euro y medio el que está repercutiendo en la contracción económica mire el

expresaba sus dudas sobre el ritmo de ajuste a españa porque

subestimaba la enorme tragedia del paro y reclamaba políticas más activas en el mercado laboral esto decía el presidente del eurogrupo mire

la escuela superior de administración y dirección de empresas alertaba esta semana del circulo de empobrecimiento que supone para la economía de las empresas y de las familias

en sanidad y en políticas sociales señor damborenea tiene usted la oportunidad de retirar esta innecesaria de mal gusto y sin alma

ha traído aquí y yo creo que sería bueno si tiene sensibilidad si le queda sensibilidad social estaría muy bien que usted tuviera el gesto noble de retirar una propuesta que ya es discutida por todos los observatorios internacionales incluso

porque ya nadie sabe cómo salir de este drama económico al que entre unos y otros nos han terminado metiendo por lo tanto la enmienda

la enmienda del partido socialista lo que pretende es señalar una dirección un rumbo de la política de la nueva política

y que se basa fundamentalmente en una cosa hay que repartir de otra manera hay que repartir mejor hay que repartir la riqueza

y repartiendo mejor en los que nada tienen hay que repartir la riqueza creando empleo defendiendo los servicios públicos y para eso hace falta dinero y mucho dinero público y para eso hay que

la política del déficit y nosotros apostamos y proponemos que se cambie la política del déficit una política del déficit que por cierto como se puede demostrar ya se ha cambiado en otros momentos se ha cambiado cuando algún país lo ha querido o se ha cambiado cuando ha habido negociaciones

de que hay que cambiarlo quienes desde las instituciones europeas apostaron por esta política de déficit hoy dicen que hay que revisarla

de la política pública como consecuencia de la retirada de tanto dinero del circuito público

un empobrecimiento oiga si usted no tiene oídos para estos problemas sociales para estos problemas de sensibilidad social si no los tiene en su partido téngalos aquí en esta cámara y le pido que retire
proposición no de ley porque es insolidaria injusta innecesaria y sin alma eskerrik asko prieto jauna

egin dira y para conseguir ese nivel de déficit pactado qué medidas debemos tomar las que toma el gobierno de madrid

cerrando empresas incrementando el paro en definitiva la economía ese no es el modelo que queremos para nuestro pueblo es más nuestra economía

potenciando el trabajo potenciando el desarrollo la innovación y el bienestar de la ciudadanía orain aste honetako berriak ikusita

arau esparrua da la parte disuasoria del pacto

que se inicia cuando el déficit rebasa el límite del tres por ciento del pib fijado en el tratado

mi grupo parlamentario comparte plenamente el principio de que por regla general

más de lo que se tiene se trata de una regla saludable y plausible de buen gobierno económico que vale o debería valer para todo con carácter general no se debe gastar aquello que no se tiene y continuaba cuando lo que es de sentido común se tiene que expresar a través de normas rígidas y coercitivas pierde absolutamente

y todo lo que tiene de común somos radicalmente contrarios a convertir las reglas del buen gobierno económico en normas rígidas que encorsetan y limitan la capacidad de actuación de los poderes públicos estrechando su margen fiscal

a los que no tienen por qué renunciar ondoren erkoreka jaunak konstituzioaren aldaketa honi ezezko botoa ematearen arrazoiak azaldu zituen

no es de recibo que se pretenda tramitar una reforma constitucional en peores condiciones de transparencia publicidad y contraste público que las establecidas con carácter general para leyes

procedimiento de lectura única para una reforma constitucional es irrespetuosa con la estructura compuesta del estado

aunque la propuesta no hace referencia a ellas se ha despreciado la comisión del concierto económico él seguía diciendo que era ineficaz porque la rigidez que supone la constitucionalización de la lucha contra el déficit

porque el artículo noventa y seis de la constitución ya establece que los tratados internacionales validamente celebrados forman parte del ordenamiento jurídico interno y por si ello no fuera suficiente otro precepto de la misma carta el artículo noventa y tres añade

garantizar el cumplimiento de los tratados de la unión europea y de las resoluciones emanadas de sus órganos terminaba diciendo que es una reforma claramente antieuropea porque lo que lleva o lo que da a entender es que si no se llevan a la constitución no se respetan los mandatos europeos diskurtso hau

en contra de la convalidación del real decreto ley por el que se introducían diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit porque discrepábamos y discrepamos profundamente en la decisión adoptada por el gobierno en relación con la amnistía fiscal

el partido nacionalista vasco comparte plenamente el principio que decía antes de que por regla general no debe gastarse lo que no se tiene pero también consideramos que no era necesario constitucionalizar la lucha contra el déficit como ustedes lo hicieron que no debería aplicarse

que se ha despreciado a la comisión mixta del concierto económico amaitzeko gogoratuko dut aste honetan gatzagaetxebarria sailburuak

gracias presidenta creo que voy a ser breve en esta ocasión lo cierto es que no sé si es una iniciativa

inicialmente planteada por el señor damborenea con alma o sin alma pero lo cierto es que lo que se decía en ella era pues que había que cumplir la ley y nosotros estamos de acuerdo se proponía

a cumplir los objetivos de déficit público acordados que es básicamente lo que dice la enmienda transaccional y nosotros estamos de acuerdo con este planteamiento

de esa enmienda transaccional para que no quede duda de que efectivamente upyd está a favor de que el gobierno de españa y las diferentes comunidades autónomas

de déficit que efectivamente ya se pactó y se negoció en su momento hay que recordar que los déficits no son gratuitos si no que terminan pagándose

elevados lo cierto es que nos guste o no no hay alternativa posible a reducir los déficits hay que reducirlos porque nos jugamos ni más ni menos que la consolidación de las cuentas públicas y ni más ni menos que el propio del bienestar y por lo tanto ese es el planteamiento que hacemos nosotros efectivamente otra cosa son las políticas que se aplican para cumplir el déficit se nos marcan una serie de objetivos desde europa y desde españa y a partir de ahí cada administración debe decidir

se aplican y efectivamente para cumplir estos objetivos de déficit se pueden impulsar recortes sociales se puede impulsar el recorte

inversiones necesarias se puede reducir educación o sanidad que es lo que habitualmente se ha hecho lo que se ha hecho durante los últimos años en españa y en euskadi

otro tipo de políticas que son las que nosotros defendemos se puede luchar más y mejor contra el fraude fiscal se puede reducir el entramado

especialmente desde el gobierno de españa y especialmente desde el gobierno de mariano rajoy en los últimos

desde luego el cumplimiento del objetivo de déficit es perfectamente compatible con el impulso de políticas expansivas y justas y con el mantenimiento del estado del bienestar

que es un medio no un fin y a la vez seguramente es algo insuficiente pero en todo caso

es decir cumplir el objetivo de déficit no es

como algunos tratan de vendernos impulsar recortes sociales decir que sí hay que cumplir el objetivo de déficit no es decir sí a los recortes que ha impulsado el gobierno de zapatero o el gobierno de rajoy o el gobierno

en absoluto y nosotros efectivamente somos partidarios de impulsar otro tipo de políticas ahí está el asunto

para cumplir esos objetivos reformar el entramado institucional reducir nuestro sector público o administración paralela hacerla más eficiente reformar la fiscalidad hacerla más justa más progresiva impulsar la actividad económica ayudar a nuestras empresas

apoyar la internacionalización mejorar la educación luchar contra el fraude fiscal esto también son políticas que a corto

harían posible que pudiéramos cumplir el objetivo de déficit para tener unas cuentas mas saneadas por lo tanto y en conclusión

y criticamos las diferentes políticas de recortes sociales impulsadas especialmente por el gobierno central en los últimos meses y en los últimos años pero desde luego

el objetivo de déficit y por eso votaremos a favor de esta transaccional que por otro lado es una obviedad gracias eskerrik asko maneiro jauna

señor prieto yo cuando usted empezaba a decir que era innecesaria pensaba que me iba a decir como ustedes se encargaron

de grabarla en la constitución española y hacerla obligatoria para todos era innecesario traerla aquí pero veo que no

y no por ese motivo que se ha dicho y como le he recordado el grupo nacionalista vasco entre otros

que había que hacerlo a todo correr y que había que apoyar a españa y al gobierno de españa en estas tesituras y

esa reforma constitucional que no solo consagra los objetivos de déficit que ustedes habían negociado

porque lo que les estaban exigiendo a ustedes en europa

era que pusieran bien clarito en la constitución española que los bancos extranjeros iban a cobrar su deuda antes que los pensionistas españoles

y que esa deuda era preferente a cualquier otra esa es la segunda parte de esa reforma constitucional

la iniciativa nuestra a la vista de su discurso es evidente que sí a usted hay que recordarle lo que ustedes han hecho lo que ustedes han propuesto bueno y lo de mal gusto pues bueno eso es cuestión de cada uno

salvajada la política que se está haciendo pues la que acordaron ustedes en bruselas

y luego me dice sin alma sin alma

alma luego le voy a explicar esto del alma mejor alma tenían las arcas públicas españolas cuando

mucha alma y como tenía mucha alma esas arcas públicas a lo mejor dejamos demasiada alma

y como no debían porque se dejo mucha alma en esas cuentas

de rescatar el sistema de pensiones que lo habían dejado me dice usted para qué hay que cumplir los objetivos de déficit

de todas formas se lo voy a explicar para qué hay que cumplir los objetivos de déficit aunque no estuvieran en la constitución

de alma usted en su último párrafo decía que queremos que españa pague la misma deuda que alemania

del partido socialista porque pagábamos el mismo tipo de interés que alemania

además del pase del partido socialista por el gobierno de españa pues por eso hay que cumplir los objetivos de déficit como se cumplieron para entrar en el euro y pagar los mismos intereses que alemania pues ahora hay que volver a cumplirlos para pagar los mismos intereses que alemania

que podríamos destinar a ayudas sociales si el gobierno pertinente que lo tiene que gestionar lo decide así

si el gobierno pertinente que lo tiene que gestionar lo decide así porque cumplir el objetivo de déficit no implica en ningún caso que tenga que haber recortes sociales de ningún tipo y yo le tengo que decir una cosa me dice usted si yo les voy a ayudar a robar a los pensionista porque ahora

yo no les voy a ayudar a ustedes a robar a nadie y yo a usted le sigo haciendo la siguiente pregunta dónde están los catorce mil ciento treinta millónes de euros de la seguridad social que no están

y que no están y le quiero decir una cosa mire usted ni yo ni mi grupo le dijimos al gobierno socialista del señor lópez que cerraran ningún ambulatorio en el país vasco eso sí con mucha alma pero nosotros nos les dijimos que lo hicieran nosotros no les dijimos

eso sí con mucha alma pero nosotros no se lo dijimos que lo hicieran nosotros no se lo dijimos nosotros no les dijimos a ustedes que en educación

que se están haciendo en españa y que ustedes los hicieron aquí un año antes con mucha alma

controlar el déficit nosotros que no tenemos alma nosotros nos encargamos por lo visto nos toca el ciclo histórico aquí consiste en que pasan ustedes lo arruinan todo y luego tienen que venir los demás a arreglarlo y cuando está arreglado vuelven ustedes y se vuelve a desarreglar todo esperemos que en la siguiente vez tarden algo más en llegar y le tengo que decir mire usted en la época de aznar que se me está acabando el tiempo tuvimos que hacer una ley para garantizar las pensiones porque las habían dejado como las habían dejado quebradas

crear el fondo por ley solo le voy a recordar que cuando llegó el señor zapatero y se encontró dinero en la caja

y gracias a dios no tenía mayoría absoluta para hacerlo en está primera legislatura porque hoy no habría nada y le voy a decir cómo va a terminar la época

y ahora tendremos que hacer una ley que garantice que los responsables políticos que quiebren administraciones y países cumplan con esa responsabilidad donde deben que es en la cárcel

señora presidenta esta mañana el lehendakari hacía unas declaraciones en las que decía que era absolutamente necesario y urgente acometer en el año dos mil trece la reactivación económica

razonable sino absolutamente necesaria ahora la pregunta es

con este déficit con el precio que soportamos para pagar la deuda con la caída de la recaudación en ausencia de una política fiscal

y traer todas las cosas que hacía que dejaba de hacer aquí tenemos un debate actual

una defensa numantina del déficit como le he dicho de forma innecesaria con mal gusto y sin alma porque a estas alturas

fíjese el vicepresidente de la comisión y responsable de asuntos económicos de la unión europea hace unos días dijo

porque sabe que es absolutamente imposible con ese déficit poder atender a las políticas de necesidad que tiene la ciudadanía

indocumentado una vez más viene aquí y no no hay ninguna flexibilidad por ningún lado

que en esta comunidad autónoma no es necesario hacerlo en esta no es necesario y el gobierno actual lo sabe el anterior también el actual lo sabe en esta no es necesario hacerlo sin embargo fíjese estimación del déficit ya para este año de los cumplimientos del objetivo del déficit en valencia

en murcia el tres coma cuatro en castilla la mancha el cuatro y hace dos días hace solo dos días la comisión europea anunció que españa no cumpliría su objetivo del déficit

a traer los recuerdos de no sé sabe dónde para luego incumplir

cómo pueden incumplir en tantas comunidades autónomas cómo pueden incumplir el déficit y luego venir aquí a dar lecciones a los demás donde realmente no hace falta mire no es verdad que no hay que gastar lo que no se tiene

porque si no hubiera que gastar lo que no se tiene

porque si hay países que pueden devolver su deuda al uno por ciento nosotros no tendríamos por qué pagar al seis

a la que le faltan controles a la que le faltan medidas a la que le falta alma para poder hacer una política en beneficio de la ciudadanía

que tiene dificultades económicas se le saca su dinero para los especuladores y para obtener beneficios

actividad productiva que solamente salen de la actividad especulativa

eso es derrochar y ya lo que es infame es acompañarlo con una literatura con una ideología

de que todo eso hay que hacerlo así y hay que cumplirlo porque no hay más remedio oiga la política es un instrumento para transformar la sociedad para llevarla

y la política puede cambiar y modificar todas las variables económicas si se dan la correlación de fuerzas suficientes y si se da la voluntad política para hacerlo es evidente que ustedes no quieren la política para hacerla a favor de la mayoría de la ciudadanía

es absolutamente vergonzoso que alemania sea un país en el que para refugiar el dinero de otros países encima hay que pagar encima hay que pagar

desde los bancos alemanes unos intereses insoportables absolutamente insoportables que cada

más cientos de miles de parados y más dramas económicos y sociales y ustedes todo eso lo están viendo como

y encima recortando servicios públicos y diciendo que no hay más remedio que hacerlo ustedes son los que están poniendo en cuestión la sanidad ustedes son los que están poniendo en cuestión la educación ustedes son

para construir el estado de bienestar social y ahora lo que hacen es privatizarlo y hacer trampas por todos los lados para llevar lo rentable de lo público a lo privado y para hacer que aquella parte pública que es menos rentable y que tiene que ser sostenible públicamente de forma solidaria

y esto es lo que estamos discutiendo aquí una política antisocial de la derecha o una política de otro signo como la que defiende la izquierda y la que defendemos los socialistas y ríanse pero de esta sociedad es demasiado gordo como para que estén plácidamente sentados

quería comenzar con el señor damborenea que nos ha dado una lección de economía doméstica hay que pagar las deudas y hay que llevar el déficit

yo lo hago en mi familia y en mi casa pero es que resulta que vivo en una comunidad el vecino de a lado se gasta toda la pasta

los pagamos entre todos y eso es a lo que estamos ahora mismo a pagar entre todos un déficit a tener que cumplir unos límites de déficit porque otros han generado unos déficit que nosotros no tenemos señor damborenea

mucho mejor el déficit que en muchas de las casas como ya le ha indicado a usted el señor prieto en las que gobierna su partido

adquiridos con los socios europeos de acuerdo pero es que resulta que la semana pasada el parlamento europeo ha dicho que

vamos a decir cintura con sus comunidades autónomas a la hora de repartir el déficit a cumplir cosa que no ha hecho el gobierno español

la posición sobre aquellos que tienen posiciones ante el incumplimiento del déficit son demagogos porque hablan de subir impuestos ayer mismo el diputado general de su partido

se lo digo por si acaso tiene que hablar con él y por otra parte los que hablan de no pagar la deuda porque es injusta

a mí sí me parece injusto que tengamos que pagar entre todos los rescates bancarios que ha hecho el gobierno español

es bankia el banco del partido popular

caja madrid por todas las personas del sector ha sido conocida como la caja del partido popular todos los años de los que ha durado y ahí está la gran deuda que hemos tenido que pagar entre todos

al señor damborenea porque claro hasta noviembre del dos mil doce ha destinado el gobierno español

al rescate bancario las instituciones vascas tenemos que financiar mediante el cupo en la comunidad autónoma vasca y mediante la aportación en navarra

por qué si no son mis bancos por qué tengo que pagar yo

para aplacar lo que el gobierno español ha considerado oportuno y luego me hablaba con lo de los impuestos

claro solo subir impuestos y por qué no hablamos del control del fraude fiscal por ejemplo o de unas reformas

en otras ocasiones solo a la clase trabajadora no

y vamos a buscar aquellos que están defraudando porque nos están defraudando a todos señor damborenea a todos a usted también le están defraudando

pero sí que me gustaría remontarme a mayo del dos mil diez en este propio hemiciclo señor damborenea

en qué mente cabe que un gobierno que tiene el veinte por ciento del paro

techo de gasto deitzen zaiona eusko jaurlaritzak

esta propuesta del partido popular antes le recordaba que habían cambiado la constitución ustedes

tenía unos discursos pero me he confundido creo de bloque

tengo aquí congreso de los diputados sesión plenaria doce de mayo

asunto comparecencia del presidente del gobierno señor zapatero para informar de la reunión extraordinaria

financieros le voy a ir extractando frases y sé que eso a la hora de interpretar el contexto pues dificulta mucho pero frases debemos hacer un esfuerzo especial para reducir nuestro déficit el programa de estabilidad fue aprobado en enero del dos mil diez con el objetivo de alcanzar

en dos mil trece un objetivo sobre el que en estos meses hemos reiterado nuestra voluntad de cumplirlo a rajatabla esta voluntad

y de que no concebimos una recuperación económica sostenida y sostenible

de unas cuentas públicas saneadas le voy a leer otro trozo de otro discurso de un compañero suyo de partido también señor alonso congreso de los diputados sesión plenaria treinta de agosto de dos mil once asunto

de reforma del artículo ciento treinta y cinco de la constitución y el compromiso con la necesaria reducción del déficit público

exige compartir con nuestros socios los criterios de déficit estructural

en conjunto solvencia europea son discursos de compañeros suyos de partido que la verdad es que se alejan mucho del que usted ha hecho aquí

no vaya a votar a favor de la enmienda transaccional que hemos acordado para terminar creemos sinceramente que la

de la responsabilidad de todas y todos de la colaboración de todas y todos y estamos firmemente convencidos que contaremos con ella en el camino

votos a favor treinta y seis votos en contra gai zerrenda agortu denez